debemos declarar y declaramos nula de pleno derecho por ser contrarias a la directiva anteriormente citada y a la ley anteriormente citada

que imponen limitaciones a la superficie máxima para equipamientos comerciales epai hau izan daiteke bada eztabaidagarria

de segunda modificación de la ley vasca de actividad comercial y leo

el vigente plan territorial sectorial de equipamientos abrevio deberá ser sometido a revisión en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación de la presente ley y en cualquier caso antes del veintiocho de diciembre de dos mil nueve atendiendo a las razones imperiosas de interés general definidas en el artículo cuatro punto ocho de la citada directiva y teniendo en cuenta los considerandos nueve y cuarenta

entendía que existía un vacio que había que cubrir y una falta de adecuación con la normativa europea que había que cubrir sin embargo esta propuesta y esta disposición final reflejada en la ley

en diciembre de dos mil nueve que consideraba suficientemente

a incorporar las modificaciones señaladas eta erabaki honen ondorioz

irakurtzen dut epaia las auténticas razones para imponer estas limitaciones a la superficie de los equipamientos comerciales

económicas y mercantiles y por ello proscritas solo se autorizan las limitaciones que por razones justificadas e imperiosas de interés general entre como la propia sala de instancia reconoce y señala en la sentencia recurrida

a la protección del medio ambiente y del entorno urbano incluida la planificación urbana y rural como señalaba un reconocido urbanista en el blog

contamos con la doctrina del tribunal de justicia de la unión europea

interpretó que la técnica del señalamiento de dimensiones máximas de los equipamientos y las restricciones de emplazamientos pueden ser técnicas adecuadas para el establecimiento

si estas limitaciones y restricciones se estiman necesarias y son proporcionadas a tal fin y esto queda recogido en una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea de veinticuatro de marzo del dos mil once beraz bidea argi dago

comerciales tal y como pide creo una mayoría social y desde luego como pide el propio sector entre otros por ejemplo la patronal euskomer que engloba no solo a representantes del pequeño comercio sino también incluso a representantes

y que recientemente ha considerado en rueda de prensa que la confederación vasca del comercio no ve razonable

en términos bastante diplomáticos porque si se habla con representantes de otras organizaciones y con personas de base del sector comercial

bastante menos diplomáticos si tenemos claro que es posible y legal en base a circunstancias de orden medio ambiental y de articulación del territorio limitar la implantación de nuevas grandes superficies este es el momento de hacerlo

y de tomar medidas para que el roto que actualmente hay en la normativa se arregle

por la que algunos ya se han dado prisa en intentar colarse no estamos hablando de amenazas genéricas en estos momentos ya hay en marcha

y ampliar el centro comercial de garbera en donostia y creo que la respuesta

explica muy bien la posición que a través de la enmienda que han transado nos van a presentar

favorecer tanto esta implantación como otras hipotéticas en el futuro creemos que esta puerta hay que cerrar hay que cerrar la puerta a nuevas implantaciones

es posible y es legal y es solicitado por una mayoría tanto del sector del comercio como entendemos

el gobierno no había hecho ninguna declaración pública ni se había dirigido en privado a los grupos parlamentarios para explicarles su valoración y sus intenciones siete meses siete meses sin responder

del territorio por lo menos con carácter público tuvo que ser una petición de comparecencia de este grupo la que motivara que por fin la consejera accediera a dar explicaciones

por encima del pequeño comercio y de ahí su apuesta por impulsar la liberación de horarios a través de la creación

y la acción municipal además del partido que sustenta este gobierno el pnv en las principales capitales vascas

tanto en bilbao como en donostia con una gran serie de iniciativas favorables a los grandes del sector y desfavorables a los pequeños beraz guk

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a continuar con los trabajos necesarios para la obligada revisión

del parlamento y a ley hau zer da hau ez da ezer

aquí no se plantea que se vayan a implantar

basadas en los criterios legalmente reconocidos para la implantación de nuevas superficies aquí lo único que se plantea es que se cumpla la norma y se adapte a la directiva europea

eso es decir que se haga una ley con arreglo a la ley de rango superior eso no es decir nada eso deja las manos libres al gobierno

poner una nueva restricción a la implantación de grandes superficies como para terminar que hay que abrir una

que quede en este país por tanto pensamos que precisamente adolece de esa falta de precisión que nosotros estábamos denunciando y este es el momento de la precisión y la claridad

lo único que hacen es añadir farragosidad al proceso de

más visiones o demás agentes políticos o de alargas el procedimiento para que mientras tanto se puedan ir cambiando algunos planes generales en los pueblos y se pueda ir permitiendo siguiendo el modelo garbera

al sector del pequeño comercio por tanto al fin y al cabo no se plantea nada en esta contra propuesta no marca objetivos no marca plazos no marca ritmos

en esta cámara me gustaría que esta y no va a servir evidentemente la sesión de hoy para aprobar la propuesta que nosotros trajimos hoy aquí pero que por lo menos sí que sirva para aclarar para aclarar no ante mi evidentemente ni ante mi grupo parlamentario sino aclarar ante la sociedad ante los sectores interesados en la cuestión del comercio

interesados en un urbanismo equilibrado me gustaría que se aclaren las posiciones de los partidos y me gustaría que se respondiera evidentemente están ustedes en su derecho a responder o no

satisfecho me gustaría que se aclararan cuestiones simples elementales y fundamentales los partidos presentes en esta cámara son favorables

usando para ello los criterios de probada legalidad delos que se dispone sí o no

vale si lo quieren hacer díganme cómo proponen hacerlo porque si no estamos lanzando cortinas de humo estamos diciendo que efectivamente no queremos nuevas superficies pero si no proponemos si no ponemos encima de la mesa mecanismos concretos y legales para evitar esa implantación estamos diciendo o estamos vendiendo humo sí estoy a favor de que se vuelva a la situación anterior

blindajes legales pero si no digo cómo lo voy a hacer ni en qué tiempo lo voy a hacer ni en que plazos ni en qué términos pues estoy vendiendo humo y otra cuestión fundamental se van a tomar medidas para que en el ínterin es decir mientras se está tramitando una nueva normativa que nos permita establecer ese blindaje entre la proliferación indiscriminada de grandes superficies

lapso de tiempo no se produzca la instalación de nuevas grandes superficies sí o no se va a actuar a favor

de la ampliación de bilbondo quieren poner algo nuevo en barakaldo porque igual les parece que faltan

eta zuek me gustaría escuchar posicionamientos claros a mí al sector del comercio y a toda la ciudadanía interesada en un desarrollo social y urbanístico

buenas tardes señor lehendakari señora consejera parlamentarios

fijar la posición respecto a la iniciativa que ha presentado eh bildu como ya se ha dicho hemos llegado a un acuerdo de enmienda de transacción grupo nacionalista vasco grupo socialista y grupo popular se ha hecho recorrido de cuál es el origen de la iniciativa

que a día de hoy pues hemos llegado a esa sentencia que efectivamente

y es el criterio que introduce la directiva europea de competitividad en el sector comercio

económicas yo creo que está claro lo que está

cuando se aprueba la ley también del sector comercial pero la adecuación a la directiva europea

y hablaba el señor casanova de que se pueden poner restricciones medioambientales usted conoce muy bien los argumentos que se expusieron a la normativa catalana

pero esos argumentos medioambientales tienen que ser muy concretos con una explicación clara y concisa

situaciones porque la normativa catalana

y no fueron tenidos en cuenta porque no era suficientemente considerados o no fueron por la unión europea por lo tanto no

propone en dos líneas en dos líneas eso no se concreta esto tiene bastante más profundidad

en decir que hemos llegado aquí después de que una ley del dos mil ocho de esta cámara decía que había que modificar el pts

y no se hizo de igual manera que no se han hecho

del no cumplimiento de las leyes eso que tanta gracia a veces les hace a los señores consejeros cuando les recordamos que no están cumpliendo un artículo de la ley

pero bueno creemos que la obcecación del gobierno en su momento

a la mercantil y la obcecación pertinente y sí que ha seguido nos ha llevado a esta situación

tres de septiembre y tiene razón el señor casanova cuando dice que el tres de septiembre

efectivamente pero no se ha hecho estamos en un gobierno zen

actuar no actuar no vaya a ser que alguien se moleste y eso es lo que tenemos esa es la realidad y es lo que ha permanecido en todo este

patrimoniales que va a ser el gobierno el que va a tener que responder pues con el dinero de todos de todos los contribuyentes

de las necesidades por detrás de los problemas pero también es verdad que en estos momentos y en esta situación pues hay que intentar modificar el pts y adaptarlo a la directiva europea que tiene que ser de acuerdo con los sectores usted puede hablar con el sector pues el gobierno para modificar el pts tendrá que hablar con los sectores o no

y tendrá que hablar con los ayuntamientos que al final son los que tienen que trasladar a su planeamiento urbanístico

por lo tanto creo que estamos aprobando algo de sentido común que es tarde totalmente de acuerdo que esto se podía haber

que ya cuando la mercantil hace el recurso ya se sabe que algo no se está bien que en el dos mil nueve alguien dice que

pero es que yo creo que no es momento de mirar para atrás

hoy tenemos un problema encima de la mesa y desde luego cuanto antes lo resolvamos estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser así

tiempo para avanzar mucho en ese trabajo pero no se ha hecho y es lo que tenemos no tenemos otra cosa

el señor casanova ha venido aquí con su verdad como siempre nos ha dicho que viene

social solicita que no se implante

eso ha dicho usted en nombre de la mayor parte de la sociedad vamos a ver el resultado que sale hoy

en base a ustedes en base a unos temas muy concretos que no responden más que con la pregunta

hemos venido a hablar sobre la sentencia que anulado las diversas disposiciones de la pts del suelo para actividades económicas

para ejercer la libertad de establecimiento a pruebas de necesidad económica

a objetivos de programación económica sententzi

eta gaur berriro ere hitzez esan duzun bezala en su justificación decía esta situación no la aprovechan únicamente las empresas

partidos ayuntamientos por qué no concretan más siempre nos ponen bajo sospecha digan claramente

desde hace tiempo desde luego si se refiere al partido socialista yo voy a ser claro en esto

lo que hacemos siempre vuelvo a decir lo que no hacen ustedes

de san sebastián hoy actualmente gobernado por el pnv con eneko goia de alcalde

el proceso se ha iniciado con la exposición pública de un convenio urbanístico entre el ayuntamiento y la propietaria garbera

y posibilitar la ampliación del centro comercial y la propiedad asume diversos compromisos

guipuzcoanos al año según la hipótesis lo que supondría unas ventas estimadas anuales de más de veinticuatro millónes de euros

estos clientes franceses compras en estos establecimientos de esta enseña en la ciudad y que gastan

en la justificación cometéis un error un error o un olvido o

planteáis que la situación supone una gran amenaza para los pequeños comerciantes

que supone una amenaza para la adecuada ordenación del territorio para el medioambiente y para el medio urbano el convenio que he mencionado antes

habla entre otras cosas habla entre otras cosas de las medidas medioambientales

para reducir los consumos estrategias energéticas pasivas utilizar diferentes alternativas de generación de energía reducir las emisiones de ce o dos y luego en otro apartado habla

local y también habla que para el desarrollo del comercio para el pequeño comercio de donostialdea

para los barrios adyacentes como son intxaurrondo y altza al promotor

y que será la sociedad de fomento la que gestionará esta cantidad y en esta sociedad de fomento están también representados

en san sebastián porque están representados todos los grupos municipales de san sebastián

señor casanova voy a intentar responder a sus inquietudes y

que en euskadi exista una libertad de establecimiento absoluto para los grandes

no ha habido desidia por parte del gobierno el gobierno entendía

el gobierno ha defendido los intereses del pequeño comercio como digo hasta el final y no existe ninguna desprotección del pequeño comercio ni tampoco se va producir ningún destrozo en el territorio como usted nos augura en este sentido hoy mismo en getxo la consejera de desarrollo económico

pero vayamos al fondo de la cuestión

casanova son dos recientes sentencias del tribunal supremo vinculadas entre sí

que han puesto de manifiesto la compatibilidad de la normativa reguladora

con la normativa europea que regula la libertad de establecimiento esta sentencia es del pasado septiembre como se ha indicado han declarado

que tenía la finalidad de proteger al pequeño comercio deben ser eliminadas de nuestro ordenamiento jurídico el tribunal supremo ha establecido que las determinaciones contenidas en este pts

en base a criterios de orden económico y como cuestión previa hay que hacer una breve referencia normativa enjuiciada en la sentencia y en primer lugar hemos de decir que se trata de un plan que como se ha dicho ya fue aprobado en el año

dos mil seis barra ciento veintitrés del parlamento y el consejo del doce de diciembre del dos mil seis relativa a los servicios de mercado interior directiva que como se ha dicho fue traspuesta en nuestro organismo jurídico mediante varias leyes

entre otras en la segunda modificación de la ley de actividad comercial siete barra dos mil ocho también se ha dicho el mandato de disposición final tercera que no voy a repetir que la doy por reproducida

la directiva europea lo que hace es prohibir que se pueda condicionar el ejercicio de la libertad de establecimiento al cumplimiento de criterios económicos

sobre la base de las denominadas razones imperiosas de interés general el gobierno vasco entendió que la trasposición de la directiva de servicios se había realizado correctamente y que la regulación en materia de equipamientos comerciales era

realizar ningún cambio al respecto en este sentido el veintidós de diciembre de dos mil nueve el consejo de gobierno de aquella época

y la directiva y consecuentemente que no es necesario realizar ninguna adaptación entre ambas normativas como digo en este escenario el tribunal supremo ha dictado dos sentencias una sobre el plan general de organización urbana de donostia y otra también sobre esta decisión del consejo y en ambos actos

y al ayuntamiento de donostia y posteriormente ante el tribunal supremo que revoca este primer fallo y manifiesta que no existe tal adaptación del pts a la directiva

jurídico estatal y autonómico declara nulas de pleno derecho el acuerdo del consejo de gobierno y de forma indirecta las determinaciones del pts que imponen limitaciones a la superficie máxima

por vulnerar el ordenamiento jurídico sin especificar

manifiesta el tribunal que en el pts se utilicen criterios económicos para la regulación de la materia pero no los identifica

cuáles son ordena también la sentencia que se publique en el boletín oficial del país vasco la parte dispositiva y determinaciones declaradas nulas cabe recordar que sobre este asunto también lo ha dicho el señor casanova se produjo la comparecencia de la señora consejera de medio ambiente y política territorial en comisión

en el que se explicaron las dificultades con que se encuentra el gobierno para identificar y determinar los aspectos del pts que resultan afectados por la anulación así mismo especificó los pasos que pretenden dar al respecto y ahora lo que procede es ejecutar la sentencia en sus términos procede ponerse manos a la obra

y procede hacerlo teniendo en cuenta los criterios generales contenidos en las leyes y en la jurisprudencia del tribunal de justicia europea al respecto

que las medidas que pueden obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento deben reunir una serie de requisitos que se apliquen de manera no discriminatoria

que sean adecuadas para garantizar la realización del objeto que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para conseguir este objetivo a nuestro juicio las medidas que debe elaborar el gobierno

en razones imperiosas de interés general tales como la ordenación del territorio la protección del medio ambiente y la protección de los consumidores

necesidad y proporción en definitiva que las razones imperiosas de interés general

relativo para este caso concreto que las previsiones normativas que realice el gobierno para los emplazamientos de esas actividades y los límites de superficie de ventas que pueden autorizarse deben justificar las restricciones que se impongan en el futuro plan territorial sectorial en definitiva que la directiva de servicios

y que la normativa que elabore el gobierno vasco debe resolver el encaje de la regulación de los equipamientos comerciales con el derecho de la unión

que la ubicación y el dimensionamiento persigue unos objetivos de ordenación territorial o de protección del medio ambiente que no siga respondiendo a fórmulas económicas porque entonces seguirá el mismo camino que lo que se ha producido en la

como se ha dicho hemos alcanzado un acuerdo entre el grupo socialista el grupo

y nosotros entendemos que eso es lo que procede en estos momentos y en ese sentido darles las gracias a los miembros

usted en su iniciativa presenta en este parlamento

y debo decirle que usted desconoce las características de estos instrumentos de planificación esto aunque hablemos de comercio señor casanova no es una tienda a la que va uno y pide

lo que no se puede pedir es elaborar un plan territorial en treinta días pregúntele si no al señor que

en qué consiste cuáles son las características y los largos procedimientos de tramitación

conocida por todos nosotros solicitan también que el gobierno pida a los ayuntamientos que no realicen modificaciones que vayan contra el pts nuevo nos parece un absurdo señor casanova con todo respeto se lo digo en primer lugar por razones de orden técnico porque los planes generales de ordenación urbana no pueden ir en contra de los

existe el llamado principio de jerarquía normativa y desde el punto de vista político porque el gobierno no puede invadir el ámbito competencial municipal

al respecto y puestos a pedir los ayuntamientos puedan abstenerse de solicitar

que a lo mejor es digamos igual al político que se refiere usted

satisfacción de algunos intereses particulares y de momento nada más eskerrik asko

señor aldaiturriaga yo efectivamente desconozco

lo que pasa que tengo por costumbre cuando desconozco un tema y me toca hablar sobre el documentarme

y por tanto no he hecho una propuesta en la que se pida redactar

un mes quizás usted desconozca las normas de la gramática y no haya conseguido entender la propuesta aquí lo que se planteaba es que se trajera por parte del gobierno vasco una proposición

por tanto no estamos hablando de lo mismo y efectivamente yo no sé si ha habido desidia por parte del gobierno vasco han pasado ya siete meses lo que no ha habido desidia es como decía antes y perdón si antes no he sido claro porque efectivamente me refería

a la hora de sacar del cajón el plan de ampliación de garbera y ponerlo encima de la mesa hay dos sentencias efectivamente pero no hay ninguna sentencia que obligue al ayuntamiento de san sebastián a hacer un convenio

plan general urbano que impiden esa ampliación pero no le obliga a realizar como decía antes con celeridad absoluta un acuerdo con garbera para la ampliación eso es fruto de la voluntad política

ver a todo un representante de un partido político que lleva la palabra socialista hacer de relaciones públicas de las multinacionales del comercio ha sido muy revelador y muy clarificador ya vemos que su modelo es un modelo ezkerraldea impulsado por su partido que laminó

local y que además ha sido un lastre para el desarrollo económico del territorio o quizás un modelo como decía una y otra vez en su exposición es el de las ciudades francesas desiertas a las seis de la tarde porque toda la actividad esta fuera de la periferia hay razones efectivamente de índole medio ambiental la estrategia vasca de lucha contra el cambio climático habla de un modelo compacto de ciudad estamos hablando del desarrollo del territorio nuestro país es en realidad un paisito

esa expresión por su dimensión que se atraviesa de lado a lado en muy poco tiempo que tiene una altísima densidad de población y por tanto es lógico que se regule y se articule

que eviten por ejemplo el que para hacer compras haya que recurrir al coche que eviten la saturación de infraestructuras de transporte en un terreno que ya está

el modelo consumo el modelo de oferta a la hora de realizar las compras tiene un impacto en la ordenación del territorio y en el impacto sobre el medio ambiente y

con una trama comercial que mantenga la vida y la actividad en esas ciudades que sacar toda la actividad al extrarradio y tener ciudades muertas modelos urbanos desérticos modelos urbanos que no son al que nosotros aspiramos por tanto es obvio que hay razones

y de carácter medioambiental que nos permitirían establecer esas restricciones a la implantación de

es evidente que hay quien quiere es decir es una decisión política y me parece bien que se defienda abiertamente es una decisión política el ponerle una alfombra roja a garbera si es que algunos la han publicitado

yo creo que es importante que se sepa quien está a favor del pequeño comercio y quien está a favor de las grandes superficies porque no se puede estar a favor de las dos de garbera la cara b de las ampliaciones de las grandes superficies es el cierre del pequeño comercio

la representación de la mayoría de la sociedad yo cuando digo que hay una oposición generalizada a este modelo comercial me baso primero

como de los sindicatos como de organizaciones de consumidores que reiteradamente se han manifestado en contra de este modelo de grandes superficies pero ademáslo han hecho no solo envase a su propia opinión sino también a estudios y a encuestas no tengo aquí en ordenador pero se las facilitará gustosamente

en cuanto horarios por tanto pensamos que están trabajando algunos para el servicio

de habilitación de actividades para uso terciario no se estaba pensando en grandes superficies porque existía un pts que impedía la creación de esas grandes superficies y el ayuntamiento una cosa es que dedique actividades

otros modelos de actividad económica que no sean exclusivamente de carácter industrial lo que no ha hecho el ayuntamiento es llamar o poner la alfombra roja a hacer estos convenios como están haciendo en donostia

que por muchas bonitas palabras que se digan a favor del pequeño comercio los partidos que se niegan a afrontar esta cuestión y esta reforma

para volver a la situación anterior están trabajando no sé por qué razones pero están trabajando como agentes
de las grandes superficies y de las multinacionales del comercio eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko berriro ere mahaiburu anderea usted ha dicho señor

de que la mayoría social está a favor saltoki handien eskaera asetuta dagoelako hori aipatu duzu

señor casanova cuando le escuchaba a usted me ha venido

que decía su entrenador dime algo que no sepa porque todo lo que usted ha dicho aquí

y en ese sentido usted ha hecho referencia a que en la sentencia del tribunal supremo se apoya en la ley diecisiete creo que es del lo tengo por aquí apuntado la ley estatal

ómnibus y debo decirle en ese sentido que efectivamente la ley diecisiete barra dos mil nueve debo decirle que en los artículos diez y once

dice expresamente se establece la prohibición de regular el acceso a una actividad por razones imperiosas de interés general

pero además añade que no se puede supeditar el acceso por límites de población o distancia entre prestadores ni invocarse

en ese sentido debo decirle que no hay ninguna desatención al sector ni tampoco

en el territorio y debo comunicarle que en la reunión de ayer de la comisión

se adoptó una serie de acuerdos de criterios interpretativos hasta la aprobación definitiva de esta revisión
en el que se han identificado las partes del pts que se anulan se van a publicar en el boletín oficial del país vasco isiltasuna mesedez y en la web del gobierno y esto es muy importante señor casanova porque

se mantiene la obligación de solicitar informe previo en los ayuntamientos sobre la adecuación

digamos la licencia municipal al pts antes de obtener la pertinente licencia

o semanas a lo máximo seguramente el consejo de gobierno adoptará el acuerdo de iniciar formalmente el proceso de revisión del plan territorial sectorial y respecto

al asunto de garbera señor casanova y esto me parece que lo va a entender usted perfectamente

demás resoluciones de los jueces y tribunales esto conforma lo que

y las sentencias se ejecutan en sus propios términos y todos estamos obligados a colaborar en ella

la sentencia la ha dictado una sala de lo contencioso administrativo y afecta a la propia administración pública

que si en un país no se cumplen las sentencias sencillamente es que no hay justicia y finalmente respecto a la normativa europea

muchas veces que en otras ocasiones que ser europeo supone participar en un club un club en el que hay que aceptar

de que propugnemos su modificación esto viene a cuento o me parece interesante que una reflexión ahora que

que quizás tengamos que revisar nuestra práctica urbanística para adaptarla a las directivas de servicio en ese sentido le animo a participar en la citada ponencia

gracias señora presidente arratsalde on señorías

empresarial en euskadi algo que han puesto de manifiesto muchos portavoces y responsables de organizaciones empresariales crece a medida que se comprueba que los indicadores sobre emprendimiento no arrojan los datos que quisiéramos y nos colocan muy por debajo de la media nacional y prácticamente

autónomas desde luego cada vez dejamos más atrás el mito de los vascos como

son muchos los argumentos que se barajan para justificar o explicar estas faltas de iniciativas y de vocaciones empresariales

universidades fundaciones que nos están alertando sobre esta

ahí están los datos y los informes más relevantes sobre este asunto y nos describen una realidad en la que el gobierno vasco sé que está preocupado sé que

pero no debiera hacerlo solo desde el punto de vista de la promoción económica sino que también debiera darle una trascendencia sociológica cultural y educativa de mayor magnitud porque tenemos que contribuir a cambiar la tendencia social hay que prestigiar

a las empresas y hay que hacer del emprendimiento un valor de referencia por elección por ambición y no tanto por necesidad o porque el hecho de acabar en el paro

cualquier actividad económica este parlamento por suerte cuenta con una ley de apoyo a los emprendedores que se aprobó en la legislatura pasada

que debe aplicarse en su integridad pero aquí no acabaría las obligaciones de cualquier gobierno que esté preocupado y que cuya prioridad sea crear empleo a la hora de necesitar poner nuevas iniciativas para buscar más vocaciones emprendedoras entre los vascos y

más puestos de trabajo con este ánimo

convicción de que el futuro de la actividad económica pasa imprescindiblemente por aquí hemos presentado

ahondar en la cultura empresarial en la cultura emprendedora la iniciativa se ha

los grupos salvo el grupo de upyd y

esta iniciativa por eso no ha resultado difícil porque creo que compartimos

llegar a una enmienda de transacción que finalmente saldrá aprobada en esta sesión en nuestra proposición no de ley pedimos evaluar la ley de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del país vasco esta ley

en cuatro pilares la educación la simplificación administrativa el apoyo a la actividad emprendedora y el fomento de las redes de negocio

una legislatura después yo creo que merece la pena hacer balance sobre esta ley y también que es algo que

a propuesta del partido nacionalista vasco evaluar el plan interinstitucional de apoyo a la actividad

las conclusiones que arrojan los estudios más autorizados en esta materia justifican esta iniciativa

vascas fundaciones instituciones y administraciones

no ha logrado recuperar los índices previos a la crisis nuestra tasa de emprendimiento es del tres coma sesenta y cinco por ciento mientras que la media

es el descenso de personas que aseguran tener perspectivas de emprender una empresa en los próximos tres años era mayor en dos mil trece

con el ascenso de personas que ponen en marcha un negocio por necesidad y no por ambición o por elección el éxito economía del país vasco depende en gran medida de las pequeñas empresas no podemos esperar a que alguien de una oportunidad a muchos jóvenes

quienes creen también o que tengan intención de crear su propia oportunidad porque va a ser su mejor alternativa para encontrar empleo en el futuro

que lleva haciendo un estudio sobre emprendedores en los últimos cinco años

no solo en el país vasco también es un mal en españa

la predisposición a iniciar un negocio por cuenta propia y esto es un dato esperanzador ha aumentado en el último informe al que he hecho referencia en un seis por ciento

se habla de evaluar no solo la ley que era lo que nuestro grupo

sino también el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora pero que este plan ya recoge en su página sesenta y nueve

de la evaluación de dos mil trece aunque no se ha presentado formalmente en comisión

aprobando esta iniciativa estaríamos pendientes de que se nos remitiera también la evaluación

en ese mismo plan interinstitucional también se contempla

se puedan modificar se puedan revisar y se puedan cambiar las prioridades y las acciones también en función de los datos que vayan arrojando los diferentes informes sobre

segundo punto de la enmienda transaccional este se ha incorporado a instancias del partido socialista nosotros en nuestra propuesta original no teníamos previsto abordar el asunto de los falsos autónomos pero puesto que hablamos de cultura de emprendedores tampoco

que no se equivoquen los términos y que no se haga pasar por emprendizaje algo que simplemente es un falseamiento del mismo a través de la figura del

apartado de la enmienda transaccional ahí sí que hablamos propiamente de la cultura emprendora

interinstitucional pero que entendemos que es muy importante

están implementándose no están dando los resultados que queremos y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso que en los planes del gobierno sobre emprendizaje y sobre creación de empresas

pero que no es un tema menor y quizá también debiera hacer pensar al gobierno

hacer y realizar acciones en este sentido y me refiero al impacto del terrorismo en la cultura emprendedora en euskadi las relaciones laborales mercantiles políticas culturales entres ciudadanos han estado pervertidas

y todos sabemos el coste económico que ello ha provocado es ingenuo pensar que si

ha afectado a la cultura política de este país sin la cual no se entenderían muchos de los comportamientos políticos y sociales actuales también es difícil pensar

afectada también en sus valores en sus normas en sus referencias

significados simbólicos de no haber tenido terrorismo por eso creo que merecería la pena cosa que no se contempla hoy en ningún plan interinstitucional tomar medidas concretas que tengan que ver exactamente con esto la cultura de los valores emprendedores

y propagarse el terrorismo por tanto también ha sido un lastre para la actividad y la cultura emprendedora

que para las empresas negocios y proyectos han tenido que padecer

y sus investigaciones sobre extorsión y violencia de eta contra el mundo empresarial los estudios e informes no solo nos dan motivos

informe del gem que creo que es el informe por excelencia en el que se inspiran los planes del gobierno que la tasa de emprendimiento en euskadi

hacer del emprendizaje una opción gratificante y atractiva pasa por muchas medidas pero si todas ellas se llevan a cabo en un contexto cultural más favorable y proclive al emprendimiento todas las medidas serán más eficaces de lo que son ahora las organizaciones empresariales con más o menos locuacidad nos alertan de la escasa cultura emprendedora

profundizar en ello por tanto multiplicaría sin duda los resultados de los esfuerzos

de manera interinstitucional pero que todavía no dan los resultados que necesitamos para garantizarnos a medio plazo la creación de trabajo a través
de nuevas empresas gracias eskerrik asko ruiz andrea

ginateke por qué hace referencia

la ley de emprendedores y bueno nosotros no estamos muy de acuerdo con esa ley pero por otra parte sí que

hace referencia también a traer los resultados del plan

lógicamente no vamos a hacer en contra de ello nos parece interesante también conocer bien los resultados en el segundo punto votaríamos a favor porque

las inspecciones en este sentido pero también aquí habría que remarcar que no solamente en dirección

fortalecerse y realizar más inspecciones y en el tercer punto

también votaríamos a favor para terminar también me gustaría

bultzatzea ezinbestekoa da horregatik el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora guk ere sartu genuen

antes de empezar con el turno sí me gustaría porque se trata de un debate sobre emprendimiento y creo que es el momento también de expresar el apoyo y la solidaridad al grupo socialistas vascos con los trabajadores y trabajadoras de la empresa arcelormittal

que también tienen sus actividades anexas a lo que supone la pérdida de puestos de trabajo en arcelormittal por lo tanto vaya nuestro apoyo y solidaridad

el veintitrés de junio aparecia en los medios de comunicación una noticia que titulaba el consejo económico y social del país vasco

un mayor impacto por la crisis y una capacidad de recuperación más lenta esto respecto a euskadi con relación a otras regiones europeas similares y estas declaraciones del consejo económico y social del país vasco se basaba en un estudio que recogían datos de la etapa precrisis y otros en plena crisis en el propio país vasco

regiones con un elevado peso de la actividad industrial orientadas a la innovación

y muy abiertas al exterior y a raíz de ese estudio el ces

orientar de manera eficaz el emprendimiento y poner en marcha foros de participación público privados el estudio del consejo económico y social del país vasco indicaba que el tejido empresarial

y que predominan las empresas de pequeña dimensión aunque el cuarenta y siete por ciento de los empleados y empleadas lo está en una empresa con más de cincuenta trabajadores y el emprendimiento en euskadi es inferior a la media española con una tasa del cuatro coma cuatro por ciento

entre las conclusiones del consejo económico y social para afrontar el futuro se encuentra la necesidad de una mayor concienciación social en torno a la necesidad de una estructura empresarial fuerte

y capaz de crear y mantener niveles de valor añadido y de empleo de calidad ese informe

un nivel de emprendimiento reducido que trae como causa según el propio consejo económico y social

y a perder el patrimonio y esto es especialmente grave cuando el emprendimiento es uno de los elementos clave

empresarial además se destaca que una buena parte del emprendimiento que se produce en euskadi

no en valoraciones de oportunidad lo que a su vez puede justificar esos niveles de fracaso de las experiencias emprendedoras vascas esas circunstancias

deben de ser tenidas en cuenta desde las instancias públicas a la hora de diseñar políticas de fomento de emprendimiento es necesario seguir apoyando el emprendimiento pero lo que resulta esencial es que ese fomento se oriente de una manera eficaz y se concluye en el informe que son necesarias las iniciativas destinadas

entre la población entre profesores entre estudiantes y también las destinadas a difundir la importancia del emprendimiento y de las actividades empresariales para la economía y la sociedad y con ese espíritu presentamos los socialistas vascos nuestra enmienda original

que hemos transado con el partido popular y con el partido nacionalista vasco los socialistas estamos de acuerdo en la necesidad de promover el desarrollo de la cultura del emprendimiento y en alentar la formación en el ámbito educativo y en la sociedad en general por eso compartimos la necesidad de estimular el espíritu empresarial

hasta los estudios terciarios incluyendo actividades de emprendimiento en el proceso educativo vasco y apoyando además el desarrollo de acciones de difusión general del emprendimiento empresarial

no tanto un problema de cultura emprendedora sino más bien un problema de no considerar el emprendimiento como una oportunidad sí nos parecía necesario seguir adoptando medidas de impulso y fomento del emprendizaje hoy se nos presenta un debate y se nos propone un debate para fomentar la cultura del emprendimiento

y que en su concepto básico compartimos la mayoría de los grupos parlamentarios aquí presentes

de la evolución de las medidas puestas en marcha antes de hacer nuevas propuestas y por eso estamos de acuerdo con el primer punto de la enmienda transada los socialistas compartimos ese mismo espíritu

cuestiones relacionadas con el emprendimiento que en otros momentos también hemos aprobado en esta misma cámara y que sin embargo no han llegado a cumplirse o a ponerse en marcha hace año y medio celebrábamos una sesión monográfica sobre cómo abordar una estrategia integral

en aquel momento los socialistas vascos pusimos en evidencia situaciones de falta de acompañamiento y orientación y de precariedad que también se pueden derivar en las iniciativas emprendedoras

que paliaban esas situaciones estimábamos entonces y estimamos hoy que el apoyo al emprendimiento no puede quedar solo en la convocatoria y adjudicación de subvenciones

porque la realidad no ya la que se refleja en las estadísticas

que no son más que personas excluidas de la contratación por cuenta ajena en la mayoría de los casos

respondiera fundamentalmente a mandatos de esta cámara no desarrollados en todas sus posibilidades

el acompañamiento la orientación adecuada de los proyectos y sobre todo a las nuevas oportunidades de negocio de trabajo con valor añadido y de vigilancia para evitar fraudes

y porque en aquella sesión monográfica sobre el paro y pobreza hablábamos de emprendimiento

a que en sus programa de apoyo al emprendimiento que permiten generar puestos de trabajo

acompañase el proceso no solo con la concesión de una ayuda

que facilitase la consolidación del proyecto con el fin de limitar los fracaso

porque la formación de emprendedores y emprendedoras no consiste solo en enseñar a poner en marcha y a dirigir un negocio la clave del emprendimiento esta en alentar el pensamiento creativo

del rendimiento otra de las resoluciones que aprobamos en el parlamento vasco instaba al gobierno a elaborar en tres meses un plan específico para el refuerzo de la inspección del trabajo

orientados a la lucha contra el empleo sumergido las jornadas abusivas los falsos autónomos y cualquier otro tipo de vulneración de la legalidad y lamentablemente aunque los socialistas hemos insistido a lo largo de esta legislatura ese plan

esa competencia tan reclamada de la inspección de trabajo luego no sabemos usarla para evitar fraudes como es el caso de los falsos autónomos es muy difícil determinar cuantos son las asociaciones de trabajadores indican que puede haber según los últimos informes

falsos autónomos en españa en cualquier caso son decenas de miles de personas que debiendo formar parte de una plantilla en cambio se ven obligados a darse de alta como autónomos simulando un aumento de empresas que no es real

un fraude y elementos como la tarifa plana de la cotización para impulsar el emprendimiento vendida por el gobierno por ejemplo de rajoy como el bálsamo de fierabras lo que el realidad ha facilitado es la extensión del fraude de los falso autónomos y así ha acabado el plazo de dos años

se acaba generando un gasto imprevisto y un problema para las personas que se habían declarado autónomas si queremos abordar con rigor el emprendimiento si queremos apoyarlo es importante dar visibilidad a estos problemas hablar de estos asuntos y de cómo discriminar las iniciativas reales de emprendimiento de aquellas acciones empresariales que esconden otras cosas la eficacia institucional en el emprendimiento no es tan complicada pero desde luego hay que mojarse con un plan de acompañamiento real al emprendedor o emprendedora con la eliminación del fraude y planificando sobre nuevos nichos de empleo nuevos espacios de actividad económica que puedan tener futuro

hacia el éxito y a las instituciones nos permitiría orientar mejor los pocos o escasos recursos que tenemos y que ponemos a disposición del emprendimiento

al emprendimiento del gobierno vasco se establece y articula dentro del marco de la ley dieciséis barra dos mil doce veintiocho de junio de apoyo a las personas emprendedoras

a la creación de la mesa interdepartamental de emprendimiento y también a la elaboración de un plan de apoyo a la actividad emprendedora de carácter interinstitucional

en comparativas europeas o al menos en entornos socio económicos similares de los contrario los datos no valdrían más que para una crítica política pero no ayudarían a avanzar en serio lo que se necesita ayudan en nada a hablar en positivo de este país si utilizamos únicamente de esa forma los datos hay cosas que nos preocupan del emprendimiento en euskadi por supuesto que sí nosotros no décimos que en euskadi seamos mejores o peores que en otros sitios no entramos a nuestro criterio falso debate lo que sí décimos es que en general tenemos una cultura emprendedora más sólida o con una vocación de emprendimiento más sostenible

comparadas con otros entornos socioeconómicos diferentes hay diferencias en esa comparativa que hacen con el estado como hemos podido escuchar en intervenciones anteriores

el instituto nacional de estadística este pasado nueve de marzo publicó una referencia sobre las estadísticas de sociedades mercantiles en enero de este año

se referencian sobre comercio y construcción a nivel del estado pues un treinta y seis por ciento de las empresas disueltas son referidas también a comercio y a construcción creo que es de preocupar esa rotación constante entre las altas y las bajas mismos sectores nos parece a nosotros el epígrafe de la industria en el estado queda en el octavo puesto de once

y las comunicaciones e información quedan en el último puesto las comunicaciones que tan importantes son hoy en día en el siglo veintiuno

el principal del estado son las referencias a inmobiliarias financieras y seguros con doscientos noventa y dos

ochenta y seis millónes de euros por treinta millónes relacionados únicamente

es un debate que ya hemos tenido en otras ocasiones en este parlamento al que emplazamos a todos los grupos aquí presentes en euskadi defendemos la política industrial tratamos de especializar y apoyamos a los emprendedores

y no solo a los emprendedores buscamos también alimentar el intraemprendimiento evolucionar desde dentro de las empresas que muchas veces

pueden y deben mejorar sus procesos para ofrecer nuevos y mejores servicios ser más competitivas en definitiva les pongo un ejemplo del informe que ha salido en enero del ine registra

en términos de variación anual de sociedades mercantiles

pero a la vez también lidera el ranking del número de sociedades disueltas a nivel del estado con un incremento de un cuarenta y dos por ciento con respecto

otro ejemplo valencia que últimamente lo hemos tenido muy referido en los medios de comunicación solo tiene un seis coma seis por ciento de variación

disueltas es cierto como ya se ha comentado aquí que euskadi tiene una menor tasa de creación de empresas

tenemos un siete por ciento menos de sociedades mercantiles disueltas con respecto al pasado año y detrás de ese dato hay mucho trabajo en un entorno muy complejo como todos conocemos y como estamos pudiendo ver en las últimas semanas eusko jaurlaritzak eta aldundiek

no obstante creo que sí es importante recordar hoy en este debate

el gobierno vasco y las diputaciones con el plan de emprendimiento en esta legislatura el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora dos mil trece dos mil dieciséis tras ser aprobado en consejo de gobierno y remitido y aprobado por este parlamento fue presentado públicamente el veintiuno de julio

se estableció la mesa interinstitucional de emprendimiento como órgano encargado de velar por el cumplimiento del plan para llevar a cabo su evaluación y su seguimiento

y también cinco ámbitos de actuación prioritarios que ya los ha citado antes la señora ruiz cinco ámbitos de actuación que marcarán la labor práctica a ir realizando a lo largo del periodo considerado en este plan

dos mil dieciséis se encuentran en marcha diferentes programas que apoya las nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador y tecnológicamente avanzadas tenemos ekintzaile un programa creado para madurar las ideas empresariales con un carácter innovador

perfil industrial y de servicios conexos con la industria

también idéntico similar al programa ekintzaile pero para proyectos de intraemprendimiento emprendimiento corporativo tenemos como he citado antes el intraemprendimiento es uno de los ámbitos prioritarios de actuación del plan interinstitucional de apoyo dadas las características actuales del tejido industrial

a través de los proyectos surgidos del conjunto de empresas ya existentes por ello se ha proyectado y diseñado una iniciativa de impulso

que ha contado ya con una primera edición en dos mil quince y cuyo éxito ha propiciado que en el año dos mil dieciséis se vuelva a desarrollar con mayor ambición a través

iniciativa se han celebrado dos seminarios sobre intraemprendimiento se han hecho cuatro encuentros donde

con expertos acompañamiento individualizado a empresas y apoyo a través de los programas

podemos contar o contamos con el basque fondo capital riesgo dotado con casi cinco coma cinco millónes de euros instrumento de apoyo a las empresas mediante la aportación de fondos en forma de capital social o de prestamos participativos

han sido un total de treinta y dos los proyectos presentados veintidós los proyectos aprobados y un total dos millónes ciento cincuenta mil euros aportados para esos veintidós proyectos

y tenemos el programa relevo generacional

que se diseña para apoyar los procesos de transmisión empresarial para impulsar y favorecer la continuidad de los negocios y del empleo y regular cómo no las condiciones y el procedimiento de sucesión y por último también a lo que hace referencia al punto número tres de la enmienda transaccional

a la actividad emprendedora es la denominada cultura y valores del emprendimiento se trata de una mirada a largo plazo que considera las acciones de fomento de espíritu emprendedor y de formación en aspectos económicos en aspecto de empresa y de emprendimiento que se imparte en los diferentes educativos educación básica media y formación profesional

superior la viceconsejería de educación participa y colabora con las restantes instituciones en este plan interinstitucional para poner en marcha medidas en materia de emprendimiento

son los centros educativos que participan programas de fomento del emprendimiento más de cuatro mil profesores y más de cuatrocientos sesenta mil estudiantes bukatzeko

señora corrales cuando esta portavoz y me imagino que el resto comparaba datos del país vasco con lo que puede ser la media en españa con otras comunidades no lo hago con el ánimo

tenía que defenderse dando datos y otros tipos de comparaciones y

que fuéramos los primeros en el ranking pero es que eso no ocurre y por eso comparamos esos datos también le he dicho que no todos los datos son malos y que hay cosas que podríamos también explorar y ahondar para empezar

somos la comunidad con más mujeres emprendedoras de españa a mí no me parece

el veintiséis por ciento en el caso del país vasco frente al diecisiete por ciento de media ese es un buen dato por ejemplo decía la representante de bildu la invisibilidad de las mujeres

a rosalía mera yo recuerdo en bilbao cómo se le dio el distintivo el premio alfiler de oro por parte de una de las asociaciones más dinámicas que tenemos en la villa y en el territorio que es mujer siglo veintiuno de directivas y empresarias es decir que tampoco caigamos en el tópico de

para empezar ya digo que justo me ha puesto un ejemplo en el que concretamente

premió y se le reconoció públicamente por eso que también eso es entre otras muchísimas cosas eso es también contribuir a la cultura emprendedora en este caso de la mujer emprendedora se hablaba también lo decía la señora corcuera el tema del fracaso

lo que en estados unidos está bien visto es más está mejor visto intentarlo varias veces y fracasar que tener éxito a la primera de cambio en cambio eso también es cultural por eso

los departamentos de promoción económica todas las subvenciones todo eso tendría más incidencia y repercutiría más en nuevas empresas

fuera más propicia y eso es lo que pretendo con esta iniciativa por eso

dentro del plan interinstitucional medidas en el sistema educativo pero algunas para que tengan resultados que van a ser

que intervenir no solo a través que también de la educación y de la

con más agentes de socialización promover esa cultura emprendedora que nos lo están reclamando además

es un clamor que quieren que se propague esa cultura emprendedora en cualquier caso

los grupos su buena disposición por consensuar esta enmienda de transacción y también por apoyar

de los puntos y confiemos que la evaluación que nos llegue y las que puedan llegar en el futuro a otros parlamentos lo que constaten es que mejoramos los ratios y que podemos volver a recuperar el mito de los vascos como emprendedores gracias

comentaba la portavoz del partido nacionalista vasco que los entornos comparativos deben ser similares yo al menos en mi intervención así lo hecho o lo he intentado

de una noticia que aparecía el veintinueve de junio en los medios de comunicación que titulaban el consejo económico y social del país vasco del reducido nivel de emprendimiento de un mayor impacto por la crisis y una capacidad de recuperación más lenta de euskadi respeto a otras regiones europeas similares como son baden württemberg flandes y emilia romagna regiones con un elevado peso de la actividad industrial

en una comparativa acertada con euskadi nosotros partíamos los socialistas de que la enmienda transada el análisis y la evaluación tanto de la ley de emprendedores como del plan interinstitucional de apoyo a laactividad emprendedora era necesario

siempre con un espíritu crítico pero a la vez también constructivo porque la autosatisfacción realmente no lleva a nada no es sinónimo de avance y por lo tanto ni de mejora por lo tanto

intentar tener un espíritu crítico y a la vez constructivo a nosotros a los socialistas vascos cada vez que hablamos de emprendimiento siempre utilizamos términos

acompañamiento asesoramiento porque son términos y acciones que ayudan a consolidar proyectos y a limitar fracasos y eso es importante nosotros estamos convencido de que un impulso a la cultura emprendedora y una planificación del gobierno vasco que favorezca proyectos emprendedores

aporten valor añadido será sin duda una política exitosa para la economía vasca y es importante y nos alegramos que la enmienda transada recoja la propuesta que habíamos hecho los socialistas de instar al gobierno vasco a través de la inspección de trabajo a que vigile las condiciones laborales en las que se desarrollan las iniciativas de emprendimiento y se evite

un término que lamentablemente se ha popularizado con gran celeridad en el mundo laboral propiciado por la crisis económica y que además es una práctica absolutamente ilegal que hay que combatir y por qué porque mina fundamentalmente los derechos de los y las trabajadoras

sí queríamos sacar de este debate alguna conclusión que fuese más allá de una declaración de una mera declaración de buena voluntad y por eso creemos necesario que el gobierno vasco

que emprenda actuaciones estratégicas y que su acción no se vea abocada o limitada a una mera contabilidad de cuántos negocios se abren o cuantos negocios cierran la persiana cada día
creemos que la tarea es ardua no nos cabe la menor duda pero se puede hacer muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales anderea

obedece a la necesidad efectivamente creo que eso es una de las fortalezas que tiene el efecto o el hecho del emprendimiento en euskadi que no se hace por necesidad sino porque hay una oportunidad real de negocio

de españa y esa es una oportunidad que no podemos despreciar por qué porque el emprendimiento que se hace en euskadi tiene una base si se me permite más solida es decir no es tan bueno

esto no son palabras mías que traigo hoy a este debate saben quién dijo estas palabras la señora arantza quiroga que hoy en día no nos acompaña en este parlamento

en su segunda intervención una vez de escuchado al lehendakari sobre los mismos hechos que hoy hemos tenido sobre la mesa o que han justificado

es que las oportunidades de negocio que se generen sobrevivan y generen empleo que no es tan importante cuántas se produzcan sino de qué calidad sean por eso
me gustaría recordar isiltasuna mesedez las palabras del lehendakari
a la señora quiroga el número de personas emprendedoras con más de tres años y medio de vida

en cuarta posición respecto al resto de países de la unión europea por eso he querido dar datos señora ruiz en la primera intervención

no he salido yo aquí a la tribuna mosqueada ni queriendo rebatir con usted

no es lo más importante en euskadi sino la calidad en el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora en su página veintisiete recoge

a nivel de estado también ya ha comentado usted que en euskadi estamos a muy buen nivel en cuanto a mujeres emprendedoras en cuanto a la edad por ejemplo el emprendedor vasco mayoritario cuenta entre treinta y cinco a cuarenta y cuatro años un treinta y seis por ciento y en el estado ese tramo de edad baja un veintiséis coma siete por ciento siendo el tramo de edad anterior

en el estado en este caso puede que sea un indicador que cumple con aquello que también decía en noviembre del año dos mil catorce la señora quiroga que alguien que ya ha tenido una experiencia laboral o que está más dispuesto

universitarios ya que un cuarenta y seis por ciento de los emprendedores vascos cuentan con estudios superiores casi la mitad

en el estado por lo tanto en euskadi creo que queda claro qué es lo que queremos queremos modelos de alto crecimiento de sociedades mercantiles que no son capaces de alcanzar

esas sociedades mercantiles que no son capaces de alcanzar los tres años de vida buscamos emprendedores y empresas sostenibles en el tiempo que creen valor que creen riqueza

las políticas de activación económica en euskadi funcionan el apoyo al emprendimiento interinstitucional también que hay que mejorar que se puede mejorar mejorémoslo entre todos